mikrofonoa itzalita hitz egin du que se ha bueno la habíamos traído

porque se intentó también mejorar alguno de los consensos que se habían trabajado al principio a través

del ararteko y de otros informes que han ido saliendo en las últimas semanas

explicaré en cuatro puntos y luego también hay otros tres que en nuestra opinión son muy importantes que desde nuestro grupo parlamentario seguiremos trabajando

conseguido convencer a los grupos que sustentan al gobierno

la disposición de los grupos de todos los grupos para negociar y también en nombre de isa gonzález que es la parlamentaria que debería estar llevando este punto y no yo sustituto en el día de hoy pero bueno me toca

me toca agradecer también la disposición de todos los grupos tanto los que han firmado

para incorporar distintas visiones y distintos puntos de vista a esta proposición no de ley últimamente desde hace mucho tiempo pero especialmente

se han ido incrementando los servicios de la administración pública que se iban haciendo o

la propia vacuna que se hacía en algunos casos por teléfono y había que incluso marcar el número de tarjeta sanitaria que mucha gente no era capaz o activar la bak que es una

para trabajar con la administración pública que te pide un correo electrónico que muchísima gente

no lo tiene las inmensas gestiones y

requiere cualquier gestión con la seguridad social los problemas por ejemplo que suscitó la declaración de la renta

por ejemplo con la cantidad de errores que se hizo este año y con lo difícil que era subsanarlos

online o por ejemplo aunque este no sea un ámbito de la administración pública pero que hemos traído muchísimas veces la ausencia de una banca pública que ponga a su servicio al servicio de toda la ciudadanía los servicios tanto de forma presencial como online hace que los bancos últimamente en euskadi

cerrando sucursales en barrios populares y en muchísimos pueblos de euskadi

y eso pasa incluso con kutxabank por tanto lo que

una situación relativamente fácil de gestionar para muchas otras personas más mayores o que por distintos motivos tienen menos facilidad para acceder a los servicios online con la administración supone enormes problemas en su vida

jartzen las tecnologías no son neutras y por tanto las políticas para gestionar las mismas tampoco lo son por tanto nos toca asegurar que las tecnologías sirven de oportunidad para un desarrollo sostenible y para el bienestar del conjunto de la ciudadanía

sea parcial o en nuestra opinión se podría haber ido muchísimo más adelante porque

informes que alertan todos los problemas y ventajas que por ejemplo durante el tiempo del confinamiento y después ha tenido todo el tema del teletrabajo cómo

desconectado en las primeras semanas y primeros meses del confinamiento con todo lo que tuvo que ver con la

administración online y por no decir que al principio también la administración

preparada para gestionar esa avalancha de gestiones

pero como en todo existe una brecha y aquí le hemos llamado brecha

interseccional por una parte es una brecha de edad porque hay generaciones que no están educadas en las nuevas tecnologías por cuestiones lógicas de edad

digitales y además una de cada dos personas mayores en euskadi carece de esas mismas

de personas hay una brecha de género una brecha donde hay un acceso desigual de las mujeres con respecto a los hombres

tecnologías de la información y según unesco también en esto influyen factores de la zona geográfica los propios recursos económicos etcétera y cómo no una razón de clase una razón socioeconómica en la que el poder adquisitivo

a un mejor o peor aparato ya sea un teléfono un ordenador y también lógicamente hay una brecha y también en euskadi tenemos de esto una brecha en cuanto tiene que ver al acceso a las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información mejor dicho en las zonas rurales

unos meses que las tecnologías habían ayudado a nuestras economías y a las sociedades a evitar un estancamiento total durante la crisis del covid o de la covid pero también también habían puesto de manifiesto la brecha digital que había entre los países y lo más importante también

dentro de ello y la propuesta que hacían que el futuro pasaba por progresar reducir

de cita previa para la asistencia presencial y también los servicios de únicamente

en los últimos meses en el último año y medio en euskadi y en muchísimas partes del mundo y

comentaba que él ha podido generar situaciones de desatención y desigualdad que deben ser corregidas son medidas las de la atención telemática remota que se adoptaron lógicamente forzadas por las circunstancias pero que por una razón o por otra también algunas se han quedado y es verdad que lo que tenemos que hacer y es un poco el objetivo de esta proposición no de ley y creo que podemos compartir es que hay que utilizar las tecnologías para acercar a las personas a la administración y no para alejarlas y que necesitamos que las administraciones las personas el personal funcionario también tenga una intervención humana directa en el sentido de poder interactuar con la ciudadanía porque no es lo mismo poner una reclamación a través de internet

las cosas de una forma más directa

la generalización de la asistencia telemática que por desgracia en las últimas semanas en los últimos días mejor dicho hemos conocido que se va a alargar y que se va a alargar muchísimo en el tiempo cosa que

hemos hecho propuestas durante estos meses y también las enmiendas a los presupuestos para mantener los puestos de trabajo que se generaron en osakidetza durante este año y medio para reforzar la atención primaria la atención presencial

en euskadi el ararteko entre las primeras recomendaciones que señaló también en su comparecencia hablaba de impulsar una regulación integral del sistema de relaciones entre la ciudadanía y la administración pública vasca y también una propuesta que era aplicar los fondos europeos los next generation para paliar la brecha

en siete puntos que hemos estado intentando negociar con los distintos grupos de la cámara empezando por algo que se ha quedado fuera y que

dicen es que hay un diagnóstico realizado para hacer un decreto que se va a aprobar recientemente pensamos que hacía falta un diagnóstico específico

incorporar una perspectiva de género interseccional en el mismo

a esta brecha digital e identificar los colectivos más afectados por esa vulnerabilidad digital seguiremos trabajando

y seguramente puede haber otras maneras de hacerlo que era la propuesta de crear una defensoría de las personas usuarias de los servicios electrónicos bien

pública seguimos pensando que es una herramienta necesaria la generalización del uso

va a traer lógicamente y está trayendo más trabajo

distintos servicios y pensamos que sería un salto adelante un salto cualitativo para euskadi

pensamos que podría haber sido esto que proponíamos nosotros otro tipo de servicio pero bueno ahí no ha habido posibilidad de acercamiento con el gobierno y tampoco en la carta de derechos digitales de euskadi

en sus relaciones con la administración sabemos que se va a aprobar un decreto en los próximos supongo que meses

de atención integral y multicanal a la ciudadanía y el acceso a los servicios públicos

me refiero a la del parlamento con el gobierno pues tenemos poca capacidad de acción en los decretos que aprueba el gobierno desde el parlamento y bueno pues sí que nos hubiera gustado pues como

un gesto de buena disposición a negociar los contenidos de ese decreto e incorporar mejoras

aunque bueno son limitadas las pnls porque no podemos acceder tampoco a otra modificación de los decretos

otro debate lo que sí que hemos llegado a un acuerdo son en cuatro puntos que nos parecen también muy importantes

completa que es la implementación de una estrategia de transición

garantizando además una atención a la ciudadanía de calidad integral y multicanal es lo que nosotros queremos establecer y nos gustaría que este compromiso de planificar acciones medidas y políticas específicas y evaluables

por otra parte la potenciación de los kzguneas nos parece

y la promoción de la figura de las personas empleadas públicas de las oficinas de asistencia al registro para crear así una red de asistencia a la ciudadanía que creo que tiene que ser lo que ayude a superar las brechas existentes en esta materia hay

administrativos tramitados de forma electrónica y el último que es la garantía de que los datos que están en poder de las administraciones públicas haya una garantía de

entre los mismos con el objetivo único

de favorecer la vida a la ciudadanía que no tenga que hacer los mismos trámites infinitas veces y también

estos servicios de forma telemática por tanto insisto que nos hubiera gustado un acuerdo más amplio tenemos este en esta ocasión

sacar adelante un acuerdo porque también así nos lo han demandado distintas asociaciones con las que hemos trabajado a lo que aprovecho también en nombre de mi compañera isa gonzález y de mi grupo parlamentario

por la democracia y otras asociaciones que han estado colaborando con nosotros en los últimos meses eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

muy bien muchas gracias presidenta señorías miembros del gobierno señor lehendakari le tenemos aquí hasta trabajando horas
extra hasta tardísimo miembros del gobierno se discute ahora una

en la administración digital que fue inicialmente presentada por el grupo elkarrekin podemos

como bien ha dicho el representante del grupo proponente

bien nosotros finalmente haremos un apoyo crítico a la propuesta porque efectivamente todo lo que suponga un avance en este sector en este ámbito es importante y yo creo que es importante también que salga desde esta cámara una opinión y sobre todo

en este caso al propio gobierno que es el que tiene la responsabilidad de la implementación de este tipo de medidas en primer lugar la importancia del tema de la digitalización es por todos conocida estamos

nos educamos nos relacionamos trabajamos a través

hay un proceso de digitalización también de las relaciones sociales la digitalización de lo que es el trabajo formación los mercados y por otra parte una digitalización de lo que es la administración pública hoy nos centraremos en esta última la historia esta la hemos contado y la hemos escuchado muchas veces en esta cámara queremos todos una administración moderna al servicio a la ciudadanía que le facilite la vida al ciudadano en lugar de complicársela todo esto ya lo hemos escuchado y

destaca que lo importante es tener una administración de verdad plenamente digitalizada

en este proceso vemos también como ha habido sectores de la sociedad de la población que por distintas razones pues por edad por situación económica o social quizá

las administraciones públicas son siempre muy partidarias de hacer todo tipo de actividades y actuaciones y acciones de promoción

las instituciones europeas nacionales y autonómicas nos lo recuerdan periódicamente siempre

que sea accesible para todos tenemos la estrategia de la unión europea de administración electrónica facturación y pagos electrónicos lo que se viene a llamar también el mercado único digital

en gran parte el contenido de la propuesta sobre todo la propuesta inicial y luego tenemos informes de las defensorías del pueblo tenemos un par de ellos que de hecho

de cinco de noviembre sobre la necesidad de reforzar la atención ciudadana para evitar perjuicios en situaciones tales como el covid etcétera y luego muy importante también el informe que en realidad era un resumen ejecutivo de un estudio

que se titula administración digital y relaciones con la ciudadanía su aplicación

al carro de la promoción pero a la hora de hacer efectivos estos derechos estas situaciones se recurre siempre por si acaso a cláusulas genéricas a cláusulas genéricas que dejan en las manos de la propia administración el cumplimiento o no de estos objetivos les pongo como ejemplo el artículo veintiocho de la carta de derechos digitales del gobierno central que dice el gobierno adoptará las disposiciones oportunas en el ámbito de sus competencias para garantizar la efectividad de la presente carta

iremos viendo y que se sigan haciendo cosas conforme el gobierno vaya pudiendo

se parece mucho al siguiente tema el tema del ave que siempre se está anunciando y nunca acaba de hacerse efectivo pero bueno ese es el siguiente punto del orden del día en lo que a digitalización de la administración se refiere

a las que esto a sus departamentos les afecta directamente en primer lugar hay una cosa que debería ser lo fácil que es invertir gastar en sistemas programas equipos para

que permitan el acceso de todas las personas a los servicios electrónicos y digitales

con dos medios propios de la administración vasca y luego además cada diputación foral tiene el suyo propio

pero parece ser que a las administraciones vascas les cuesta nos cuesta bastante en segundo lugar hay que garantizar un uso sencillo de las aplicaciones y los certificados digitales decía antes el señor zatón muy bien oiga es que hay personas

y sobre todo pues hay personas a las que esto les cuesta por distintas razones y los certificados digitales

o que lo han sido hasta hace poco y saben de sobra que el tema de los certificados digitales sobre todo con la administración de justicia pues es una cosa que estamos en ello estamos en ello pero es una cuestión de la que todavía queda bastante en españa hay distintos certificados digitales luego pues a veces falta interoperabilidad luego depende a qué sistema

ya lo sabemos y yo creo que esto es algo que deben evitar las administraciones porque no hay que olvidar una cosa aunque aquí

pero hay una sola administración y cuando se plantean recursos

administración la iniciativa que hoy se presenta como os decía antes

lo inicial sobre todo en una cuestión que no le gusta nunca al gobierno qué es lo que no le gusta al gobierno pues que le pongan plazos entonces claro qué es lo que ha desaparecido

los plazos aquí ya se han presentado iniciativas

y lo que nosotros vemos es que es necesario establecer plazos establecer plazos esto es como

es importante establecer plazos para hacer pero plazos razonables y creíbles oiga pues hacemos

y sobre todo donde haya un compromiso también presupuestario que curiosamente

que dejamos sin ejecutar estas partidas lo cual o parte de estas partidas

pero no tiene incentivos qué incentivos tiene el sector privado hombre la ganancia lógicamente consecuencia pues el sector privado el comercio electrónico está muy adelantado

y en cambio la parte pública la administración electrónica está en pañales esto por qué

fuerza y determinación este tipo de cuestiones a los gobiernos y entonces pues no llegan las mejoras en la administración que son las necesarias ese es el gran problema

la conclusión es que cualquier iniciativa en materia de garantizar mejor un acceso de las personas a la administración

pues porque hombre hay elementos muy importantes y hay que reconocérselo al grupo proponente y a los grupos que lo apoyan finalmente a través de la transaccional pero nos pasa lo de siempre carecemos de unos plazos y si carecemos de unos plazos carecemos realmente de una planificación seria

pero vamos a tener que seguir vigilantes para que el gobierno no abandone esta cuestión que es tan importante

sí gracias presidenta arratsalde on lehendakari consejeras
señorías arratsalde on guztioi bien hoy debatimos esta proposición no de ley de podemos

propositiva proceden literalmente del estudio que no informe estudio

su aplicación a las administraciones públicas vascas que elaborado por el profesor rafael jiménez asensio fue publicado el pasado diez de septiembre tal y como se expresa en el citado estudio

este estudio se alimenta por una parte de ingente información derivada de producción tanto intelectual como documental como estratégica y normativa y por otro lado de las respuestas a un cuestionario que se remite a diecisiete administraciones

y lo que pretende es contribuir a que los poderes públicos vascos puedan identificar problemas y buscar soluciones para mejorar las relaciones entre la ciudadanía y la administración pública desde el punto de vista digital yo creo que coincidimos todos en que se ha producido

electrónica y que las necesidades a las que nos ha enfrentado la covid diecinueve han supuesto un importante efecto acelerador

garantizar y compatibilizar el uso de los medios electrónicos para poder canalizar la participación de la ciudadanía en la actividad administrativa

y la interoperabilidad que es lo que venimos hablando cada vez que hablamos de esto efectivamente queda mucho por hacer señorías pero lo cierto es que los nuevos escenarios son dinámicos y cambiantes pero no partimos de la nada

que ya el gobierno socialista del lehendakari

dio un importante avance en la construcción de una administración innovadora abierta y participativa

a las necesidades de la ciudadanía vasca y esta cuestión forma parte de los asuntos nucleares que se han venido recogiendo en los acuerdos de gobierno firmados por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra en estas dos últimas legislaturas

se ha venido trabajando de una manera incesante y en ese sentido me permito recordarles por ejemplo el plan estratégico de gobernanza e innovación pública

que ha desarrollado las bases de una cultura administrativa basada en la transparencia la eficacia la participación y la evaluación de resultados ese plan lo tienen que recordar muchísimos de ustedes porque fue presentado en este parlamento el siete de febrero de dos mil dieciocho

preciosa colgada en irekia desde hace ya tiempo y ahí podrán constatar se ha avanzado en esta materia de manera sostenida por ir al contenido literal de la iniciativa he de decirles que como ya saben en estos momentos se está elaborando

dos mil treinta que va a establecer una estrategia de transición digital avanzar hacia una administración pública que ofrezca una atención a la ciudadanía de calidad integral y multicanal y fomente el uso de los medios electrónicos y ahí tienen ustedes muchas cosas de las que se reclamaban en la iniciativa original y de ello el contenido

del primer punto de nuestra enmienda de transacción que es la que hemos firmado y yo creo que recoge exactamente muchísimas de las cosas que aparecían en la iniciativa original por otro lado también coincidimos en la necesidad de potenciar el papel de los kzgunea

en lo relativo a la capacitación de habilidades digitales a la ciudadanía faltaría más en la que está prevista una partida con cargo a los fondos next generation y también estamos de acuerdo

empleadas públicas de las oficinas de asistencia de registro a fin de constituir una red de asistencia a la ciudadanía para superar las diversas brechas existentes y eso es exactamente lo que proponemos

en el punto segundo de nuestra enmienda de transacción aunque aquí hay que decir

y es que tenemos efectivamente la figura del funcionario habilitado creado dicho sea de paso por una orden de la entonces consejera de administración pública del gobierno socialista idoia mendia

ciudadano pueda autorizar a ese funcionario para que realice los trámites que necesite

estoy hablando por otro lado también vemos oportuno incrementar el número de servicios que se ofrecen

el nodo de interoperabilidad y seguridad de las administraciones de euskadi donde todas las administraciones y entidades del sector público vasco

original entre ellas y con el resto de las administraciones incorporando todas las opciones de interoperabilidad disponibles en cuanto al proyecto de ley que se solicita

el gobierno tiene un proyecto de atención integral y multicanal a la ciudadanía

electrónicos que está abierto a consulta previa desde el pasado nueve de noviembre y en cuanto al defensor de las usuarias y usuarios de los servicios electrónicos en fin

se presenta una iniciativa para en fin para que parezca que no se hace nada y esto no es un informe insisto es un estudio y es un estudio del ararteko que tiene muchísimo valor efectivamente pero es lo que es un estudio y de ahí

que haga falta ningún defensor del usuario entre otras cosas porque ya lo existe que es el propio ararteko y que

y para finalizar decir que también tenemos el presupuesto de este año

del departamento en el que se ve con claridad que casi un cincuenta por ciento se destina a financiar del departamento casi un cincuenta por ciento se destina a financiar la modernización e innovación e implementación de la administración electrónica transformación digital y emprendimiento y tenemos partidas relativas por ejemplo a las actuaciones pcti

cuatro millónes de euros y la partida fundamental que tiene prevista el departamento para luchar contra la brecha salarial que asciende a casi siete millónes de euros más partidas

lectura fácil y navegación accesible y todos estos datos los tienen que saber

grupo proponente de esta iniciativa pero bueno dicho todo esto lo que toca yo creo en este momento fundamentalmente es felicitarnos por el acuerdo

fundamentalmente porque si vamos a lo micro a lo mínimo pasamos de tener no sé cuántos párrafos y no sé cuántos puntos a cuatro

está en fin concentrada una parte muy importante de lo que se solicitaba y que además es una parte muy importante de lo que ya se está haciendo

póngase medallitas porque este acuerdo es mucho mejor de lo que usted

su disposición para el mismo también agradecer al resto de los grupos
que han manifestado su adhesión al mismo nada más y muchas gracias eskerrik asko gallástegui andrea

autogobierno cuenta con una viceconsejería de relaciones institucionales donde encontramos las direcciones de atención a la ciudadanía y servicios digitales o también la de gobierno abierto entre sus funciones destacan el análisis y la evaluación de actuaciones y proyectos en materia de gobernanza pública o impulsar las tecnologías que sustenten la tramitación de procedimientos por diferentes vías eso significa

y esto hace ver también cómo la apuesta del gobierno y del departamento es decidida para con la administración digital y su desarrollo gaurko

las vimos plasmadas en su momento en la iniciativa original de elkarrekin podemos que hoy debatimos y tras muchas conversaciones un par de veces que se quedó pendiente de debate

los hemos visto plasmados en el acuerdo que hoy hemos alcanzado el acuerdo transaccional yo le voy a dedicar creo que más tiempo que el que le han dedicado ustedes desde los grupos de la oposición a lo que hemos acordado y no tanto a lo que no hemos acordado que también pasaré a explicar el punto de vista de nuestro grupo y por tanto en el primer

dos mil treinta que actualmente se encuentra en fase de conclusiones es decir ya ha pasado

de cuál es la situación en la que estamos y por tanto esto está relacionado directamente con la solicitud de ese diagnóstico que se hacía y que se ha quedado fuera de este acuerdo por lo que desde nuestro punto de vista si para un plan con un horizonte dos mil treinta ya se ha realizado un diagnóstico

redundar en lo mismo incluir otro punto más de que se realice otro diagnóstico paralelo en torno al mismo por lo tanto estamos hablando de una estrategia de transición digital que

nos haga avanzar hacia una administración pública multicanal que ese es el objetivo de todo lo relativo a la digitalización de la administración que ofrezca además a la ciudadanía

que la atención que se ofrece al ciudadano a la ciudadana sea igual o de la misma calidad en la vía telemática en la vía digital como en la vía presencial

medidas identificará retos y también cuantificará cómo medirlos por lo tanto creemos que será un plan desde luego ambicioso y que más pronto que tarde conoceremos en el parlamento otro de los focos del acuerdo transaccional lo ponemos en este caso en la red que recientemente además ha cumplido veinte años al servicio de la ciudadanía en este caso

nuevas tecnologías a través de los doscientos cuarenta y uno centros que hay repartidos por toda euskadi en este sentido y en relación con este punto la solicitud que hacemos

el papel de estos es lo que solicitamos así como una promoción también y se ha mencionado por parte de otros grupos de la figura de las empleadas

que siempre y cuando la ciudadanía así lo desee puedan estar habilitadas para realizar trámites en nombre del ciudadano o de la ciudadana y desde luego eso creemos que es una figura que quizás no se conoce tanto de puertas hacia fuera de la administración y que hay que poner en valor para su uso bestetik euskarazko

por último hablamos de transversalizar la interoperabilidad y como bien ha dicho la señora gallástegui

interoperar archivos y lo que en realidad tenemos que hacer es interoperar datos para ello existe en euskadi la plataforma nisae que también se ha mencionado

tratar de transversalizar la interoperabilidad a través de esta plataforma

interoperen como digo esos datos y ampliar también el catálogo y número de servicios que se ofrecen además a través de las mismas

objetivo y reto que ha hecho suyo el gobierno vasco para esta legislatura queda trabajo por hacer si no hoy no estaríamos alcanzando este acuerdo y estamos seguros de que cada día se trabaja con ese objetivo de mejora en el horizonte lana geratzen zaigu

lehen esan bezala benetako erronka debemos continuar ofreciendo por tanto a la ciudadanía medios y vías para su relación con la administración ser capaces de adaptar los servicios presenciales los servicios públicos presenciales al medio digital manteniendo su calidad y ahí creemos que está el verdadero

el diagnóstico que no se ha incluido creo que lo he explicado anteriormente pero creemos que si ya para el pgipgb se ha hecho con el horizonte dos mil treinta un amplio diagnóstico

creemos que incluir otro punto más sobre realizar otro diagnóstico de poco valdría o sería redundar otra vez en lo mismo o destinar recursos y tiempo a algo que

ya estaría realizado también se ha hablado de la creación de una defensoría de los derechos digitales de la ciudadanía y en este caso coincido con la señora gallástegui

nosotros no somos partidarios de duplicar las que serían sus funciones y en todo caso si se diese esa necesidad lo que se podría plantear es reforzar este departamento pero desde luego no crear una entidad paralela que haga sus funciones porque para ello está el propio ararteko

se ha hablado de la carta de derechos digitales de euskadi en este caso desde nuestro punto de vista tampoco creíamos conveniente incluirlo en tanto en cuanto está en desarrollo un proyecto de decreto de atención multicanal lo han comentado varios de ustedes un proyecto de decreto que se encuentra en consulta previa por lo tanto

derechos de la ciudadanía y también los deberes de la administración en su relación entre ellas y por tanto creemos que

que el que pueda tener una carta de derechos digitales como ocurrió en el gobierno del estado y que al fin y al cabo no deja de ser un papel en el que como ha mencionado el señor gordillo también en algunos de los puntos no dejan de ser

sin entrar a demasiados puntualizaciones por lo tanto nosotros apostamos más por el desarrollo de ese decreto que sea la herramienta que garantice los derechos y deberes de la ciudadanía y de la administración en el ámbito digital
y ese sería un poco nuestro punto de vista besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

haré algunas puntualizaciones que me gustaría hacer pues por ejemplo esto de hombre rechazar lo del defensor del usuario diciendo que hay un ararteko pues lo mismo valdría para la asistencia al propio ararteko defensor del pueblo español pero en fin no me voy a meter aquí

o tanto consenso en esta cámara sobre esta cuestión animo a todos los grupos a que apoyen nuestras enmiendas para la ley del sector público

donde recogemos este tipo de iniciativas y además yo creo que la han mejorado bastante muchas gracias señorías

miembros del gobierno la llegada del ave al país vasco la verdad es que se parece cada vez más lo decía el otro día el presidente de nuestro grupo a la historia interminable

y yo creo que con escaso éxito al menos hasta el momento

y el inicio de las obras comenzó más o menos en dos mil ocho

y lo cierto es que avanzamos poco o nada

como le gusta a cierto grupo político llamarlo me imagino que por la e de españa pero total estaba la e de euskadi pues podía haber sido de alta velocidad de euskadi también pero en fin digamos el tav que es como todo el mundo lo conoce

que es la parte interna la conexión de las tres capitales el nudo de bergara la conexión con burgos que es lo que nos permitiría

y la conexión con francia empezamos por el final vamos a hacer un repaso

el gobierno de españa no está haciendo ninguna gestión con el país vecino me refiero a francia y lo que sería una obra relativamente sencilla no sé si

pues está parada para esto habría financiación europea y además una posibilidad de hacerlo de una forma yo creo

pero sin embargo no está habiendo ningún tipo de avance y además las estimaciones más generosas últimamente había un informe por ahí del tribunal de cuentas de la unión europea hablan de que a lo mejor se empieza en dos mil treinta y siete a lo mejor

además de perder fondos europeos es probable que nos haga enfrentarnos a algún tipo de sanción devolución de fondos que ya se han recibido por parte de españa etcétera en fin

que esta yo creo que es la que reviste mayor importancia práctica para gran parte de los potenciales usuarios entre los que me puedo incluir que es la que permitiría hacer bilbao madrid por ejemplo en dos horas y media vitoria madrid en dos horas y poco dos horas y diez o san sebastián madrid en dos horas cuarenta y cinco bien esto tampoco avanza realmente el otro día

quedan más de noventa pero bueno tres kilómetros y medio que pueden costar pues juntando la parte interna y quizás los soterramientos pues quizá en mil seiscientos millónes no sabemos

con el gobierno de mariano rajoy había un acuerdo con plazos y con financiación ahora no hay nada o como iré diciendo lo que hay

promesas que se van repitiendo las mismas promesas y siempre cambiando lógicamente la fecha hasta llegar a la situación actual en la que ya directamente no hay ni fecha

y la entrada soterrada en vitoria y en bilbao es el tercer gran proyecto

va avanzando pues como la canción casi un pasito

porque esto lo cierto es que estamos en una situación en la que puede parecer que hay un cierto avance pero es que cuando esto acabe cuando esto acabe y se empiecen a repasar todos los tramos que se han construido el consejero lo sabe bien

esos pequeños tramos que se han ido construyendo interiormente y habrá que a lo mejor hacer alguna cuestión alguna adaptación con lo cual lo cierto es que esto avanza no hay avances

cada vez que hay que negociar presupuestos en madrid el gobierno vasco siempre busca la encomienda de gestión que está bien lo de la encomienda de gestión encomienda de gestión señorías saben que es gastar el dinero del ministerio que también es el dinero de todos lo que pasa es que hombre la encomienda de gestión vale para lo que es el tramo interno

el problema es insisto los más de noventa kilómetros con el ramal o sea que nos tienen que unir con burgos

lo del tema de la encomienda de gestión pues está bien está bien mal bien puede ser una solución parcial etcétera bien

este no es el problema gordo el problema serio esta sin embargo es la preocupación que parece siempre

al menos hay un acuerdo entre instituciones gobierno central

es un protoacuerdo para la entrada soterrada se dice aunque no contempla plazos y solo contempla parcialmente la cuestión del reparto de las inversiones pero bueno luego hay que consignar las distintas inversiones pero tampoco contempla plazos se ve que como decía en la intervención anterior

en el caso de bilbao la situación ya es de abandono total antes de que bueno la verdad es que es por todos conocido señorías el pnv echara al gobierno de rajoy estaba clara la cuestión del soterramiento a bilbao había fechas

antes había un trazado financiación fecha de inauguración por cierto era dos mil veintitrés y ahora estamos en lo de siempre es un poco lo que podía ser el lema de este gobierno que es

tenemos un ayuntamiento que quiere que le paguen el soterramiento una diputación que mira para otro lado un gobierno vasco que se reúne con la ministra sin contar con los anteriores y esto

y luego lo arreglan diciendo que bueno que sí que vamos a hacer una cuestión una cosa y tal para acelerar la llegada

no lo sé en qué sentido y que llegará a basauri y luego pues ya iremos viendo

es una falta de liderazgo el gobierno vasco tiene que liderar este proyecto y no lo está haciendo

un tanto pero veo pocas ganas de trabajar de verdad trabajar en equipo fomentar acuerdos interinstitucionales que es lo que hace falta de verdad para sacar adelante este proyecto y que el ave

sea una realidad el pnv está descolocado yo creo que todavía tiene el síndrome del príncipe destronado

en vez de a ellos para los presupuestos y hombre algo tenían que hacer así que rápidamente el otro día

a la estación de vitoria con el portavoz en el congreso tela con el portavoz parlamentario en el congreso

la verdad es que me sentaría bastante mal a decir que ha arrancado un compromiso político a pedro sánchez

para que sea la administración vasca la que lidere la ejecución de los soterramientos que no sabemos cuándo

para que sea parece ser el gobierno vasco el que ejecute las obras hablando en plata el que asigne los contratos no bueno pues tienen una promesa de sánchez como todo el mundo sabe el señor sánchez nunca ha faltado a su palabra la conclusión de esto cuál es

hay una falta de coordinación hay una falta de coordinación absoluta entre administraciones señorías lo cual es especialmente grave en el caso de bilbao y en el caso de bizkaia

es preocupante que la disputa sea siempre por ver quién asigna las obras que todo

quién se pone la medalla vuelvo a insistir mucha gente moviéndose

de tanto moverte a lo mejor no acabas saliendo en la foto veo poca gente realmente dispuesta a remangarse de verdad a llegar a acuerdos

que nos interesa sino a todos a la gran mayoría de los grupos de esta cámara

porque claro si ya nos servimos para ser conseguidores si ya nos han quitado el puesto para qué servimos verdad

que es la que nos unirá con madrid con sevilla con córdoba con málaga

está ahí está apartada mientras el congreso de los diputados en españa se ha convertido en un zoco en el que nadie piensa en los intereses generales

va a los distintos grupos a intentar decir que han arrancado un compromiso al gobierno central de turno y luego van a su circunscripción a intentar ponerse la medalla creen que esto les está beneficiando pero en realidad esto lo único que está haciendo es degenerar cada vez más el sistema y lo cierto es que no tenemos ni tenemos ave ni tiene pinta de que vayamos a tener

es una ilusión el que tengamos internamente unas vías que puedan unir las tres capitales está bien pero es que no vamos a tener ave de verdad el ave es la conexión

que nos lleve a europa y que dejemos de ser una isla tanto con europa como con españa

insisto solo tenemos proyectos en el aire los grupos del gobierno seguro que vendrán luego a recordarnos nombres han hecho tales cosas pues los distintos gobiernos socialistas pues se critican no y los del pp tal y cual cosa hombre yo creo que ya llevan un tiempo gobernando

dejemos que intervengan y luego procederemos lo cierto es que

parece que se saca cada vez que hay unas elecciones

y aparecen los grupos de costumbre a intentar ponerse medallas

nosotros para álava lo que pedimos es poner fechas y realizar ya los compromisos económicos y presupuestarios con un cronograma de ejecución real

de un acuerdo interinstitucional pero es que en el caso de bizkaia no hay nada de esto por eso nosotros

al ayuntamiento a la diputación al gobierno vasco al gobierno de españa un acuerdo que incluya el soterramiento

estaciones temporales que ya sabemos señorías que lo temporal en españa se acaba haciendo permanente les podía recordar de cuándo es la fecha del código civil español o la ley de enjuiciamiento criminal que hombre son normas del siglo diecinueve que más o menos las estamos aplicando hasta hoy día

pero el soterramiento hasta el centro de la ciudad el aprovechamiento del soterramiento es decir qué se va a derivar de eso en el caso de bilbao por ejemplo

de ese beneficio y que revierta en la sociedad que se haga un acuerdo entre las instituciones para que eso al final acabe beneficiando a la sociedad que queden claras las aportaciones que harían cada institución y sobre todo las encomiendas oiga está bien que el gobierno haga encomiendas y por qué las hace la diputación y por qué no las hace el ayuntamiento y un cronograma de ejecución este acuerdo

además un compromiso por parte del gobierno de españa que se nos está olvidando señorías pero es que es lo más importante lo más importante es el tramo que nos va a unir con burgos que es lo que nos permite unirnos al resto de españa con el ave y concretamente también

es necesario que exista este tipo este acuerdo y es necesario que existan compromisos presupuestarios también por parte del gobierno central y además es muy necesario que el gobierno español haga algo que no sé por qué no está haciendo que es intentar llegar a un acuerdo con el gobierno francés con el gobierno de parís para que ese tramo que

a europa ahí hay unas cuestiones que habría a lo mejor que ensanchar para permitir una

de lo que serían las mercancías etcétera pero bueno hay financiación europea y eso

es que las mejores estimaciones hablan de empezar en dos mil treinta y siete el ramal francés en síntesis que con esto acabo

está afectando y mucho al desarrollo de nuestra tierra y a un proyecto estratégico que nos conecte con el resto de españa

seguiremos siendo una isla en españa y seguiremos siendo una isla en europa muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

maiatzean la alta velocidad no puede llegar de cualquier manera la alta velocidad tiene que llegar soterrada

porque dejaríamos la brecha ferroviaria que hoy existe para siempre eta

un plan b es inaceptable después de esperar tanto no puede haber un plan b este alcalde no va a permitir que se barajen otras opciones hitz horiek

sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on guztioi hoy debatimos sobre una moción a la llegada del tav al país vasco y sobre

que no les gustara lo que escuchó pero la respuesta fue más que suficiente y adecuada

interpelación era presentar esta moción y aquí estamos debatiendo

y que luego han sido trasladados al programa de gobierno para esta

indiscutible en materia de infraestructuras y transporte sostenible

convertir el transporte por ferrocarril de personas y mercancías en uno de los ejes vertebradores de la movilidad sostenible en euskadi entre otras actuaciones se culminará

y vitoria gasteiz se culminará la obra de la variante

de donostia san sebastián y se construirá el intercambiador de riberas de loyola y hay que añadir también el compromiso firme de mi partido y el partido nacionalista vasco firmantes del acuerdo de completar las transferencias a euskadi

de transporte de las materias y servicios referidos en este caso

el estatuto de gernika en el informe sobre la actualización de las transferencias pendientes y en el cronograma remitido formalmente por el gobierno de españa el veinte de febrero de dos mil veinte ello va a permitir a euskadi una gestión

del actual sistema de transportes tanto en lo que se refiere a la movilidad interna como a su conexión con territorios vecinos las infraestructuras ferroviarias son de vital importancia y en esta legislatura con el consejero arriola al frente está experimentando un fuerte impulso

vasca en los próximos años los y las socialistas creemos

es fundamental que se crea en esos proyectos afortunadamente después de algunos años el consejero arriola vuelve a gestionar proyectos que nacieron en aquella legislatura en la que fue también consejero de transportes del gobierno del lehendakari patxi lópez por tanto no tengo ninguna duda que

un nuevo impulso y en algunos casos se verán culminados no voy a repetir lo que dijo aquí

interpelación porque fue muy rotundo y claro pero sí referirme a alguna cuestión

y para llevarla adelante hace falta decisión voluntad política

inversor y tiempo y el consejero arriola no pudo ser más claro y tajante en su respuesta cuando se refirió a la y vasca como una infraestructura esencial para conectar los

con el resto de españa y europa y para poner en valor la posición estratégica de euskadi en el corredor atlántico una infraestructura que además de mejorar la conectividad tanto de pasajeros como de mercancías fortalecerá el desarrollo de euskadi y su competitividad

para que llegue a euskadi en la forma acordada por todas las administraciones es decir a través de las integraciones soterradas de vitoria gasteiz y bilbao y trabajando

por el propósito de agilizar la ejecución de esta gran infraestructura cabe también mencionar el protocolo aprobado en consejo de gobierno el pasado veintiséis de octubre y que entre otras cuestiones permitirá licitar al ministerio de transportes movilidad y agenda urbana por medio de adif

en el proyecto constructivo esta decisión consensuada

abiadura handia es algo inusual pero permitirá acelerar el ritmo de tramitación y acortar los plazos

de las instituciones que van a participar en este proyecto que tratándose de una infraestructura de país sería deseable y conveniente que contara con el mayor apoyo posible

previo e ineludible para la constitución de la sociedad que se encargará del soterramiento en bilbao un trabajo riguroso en colaboración con el resto de instituciones

mayor o de la forma más ágil posible y siempre que puede el pp también lo ha hecho aquí parece que saca a relucir la supuesta falta de voluntad

siempre coincide con los momentos en que su partido el partido popular estaba al frente del gobierno el volumen realizado

de impulsar el proyecto y quién no los últimos años del gobierno socialista

entre dos mil ocho y dos mil once el gobierno de españa invirtió en esta infraestructura más de setecientos sesenta y nueve millónes por el contrario en los últimos cuatro años con el pp y rajoy al frente entre dos mil quince y dos mil dieciocho

apenas superó los doscientos sesenta y seis millónes de euros y es a partir del año dos mil diecinueve cuando la inversión

de hecho el presupuesto contemplado por el proyecto de presupuestos del estado

está claro lo que nos dicen los datos y es que para que avance adecuadamente la inversión necesaria para acometer las obras y las soluciones en la y vasca la mejor garantía es que sigue habiendo un gobierno de españa socialista ya que este y otros muchos proyectos que se encuentran en distintas fases de ejecución y tramitación forman parte de una estrategia de movilidad basada en la intermodalidad sostenibilidad accesibilidad y eficiencia que pone en el centro de la ecuación los derechos de la ciudadanía vasca en materia de transportes y sus necesidades toda esta estrategia fue acordada en profundidad con la ministra de transportes del gobierno de españa y el consejero de transportes del gobierno vasco el señor arriola en un encuentro celebrado en lakua el pasado día cuatro de noviembre en el que se acordó el internamiento

diferentes pasos intermedios que habrá de dar en la ejecución de estas dos importantes actuaciones

del gobierno de españa en relación a la cuestión del soterramiento fue firme y así quedó reflejado en la comparecencia ante los medios que hizo la misma ministra ese día

a algunos y algunas de ustedes les pese esta infraestructura esencial para euskadi para conectarnos de una manera más rápida y sostenible con el resto de españa y con europa va a ser realidad con respecto a la enmienda que ha presentado

ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción de pp ciudadanos una moción que trata sobre

su enmienda lo que hace es una interpretación programática de lo que ha de ser una política ferroviaria en el país vasco por no hablar de las condiciones de gestión en esta materia incluidas

para el gobierno de españa que además al final la paga el estado en realidad

al acuerdo de gobierno y al programa de gobierno entre mi partido el partido socialista de euskadi y el pnv y al trabajo que se lleva realizando en materia de infraestructuras ferroviarias a lo largo de estos años junto al gobierno de españa su enmienda

político que además de irreal es imposible y es que aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid y aprovechando la moción de pp ciudadanos

de su programa político en materia de infraestructuras y movilidad sostenible y con respecto a su moción en principio

la voluntad de las administraciones vascas y española para dar impulso y avance a estos trabajos sobre la infraestructura

vía encomiendas negociaciones que se han dado ya creo que invalidan un poco la petición relacionada en la moción el camino ya está hecho y era instar y ahora no hay que hacer otra cosa más que si usted aprueba esta moción sería una reiteración innecesaria que no viene al caso como ha quedado evidenciado por los diversos encuentros políticos e instituciones

de estos últimos meses es una muestra más

el gobierno de españa están dando y van a dar a las obras del tren de alta velocidad eskerrik asko

gizartearen kohesioa eta kohesio ekonomikoa bilatzen zuen esto es integrar impulsar y cohesionar europatik irakurketa

la ubicación estratégica de euskadi en la rótula del corredor ferroviario atlántico ha sido la razón fundamental para que este proyecto tenga la consideración de estratégico y ha invitado a apostar en todos los ámbitos posibles para la ejecución y la culminación de este corredor ferroviario así el tren de alta velocidad

ha llevado a cabo en madrid en todas las negociaciones de los presupuestos generales del estado se ha utilizado se ha negociado este aspecto

que sean y hemos intentado siempre que nuestra presencia en madrid

diferentes que consiguieran impulsar la infraestructura haciendo prácticas de cogobernanza en nuestro territorio y buscando herramientas que permitan una mayor estabilidad y eficacia en el desarrollo del proyecto

esta necesidad planificadora se consolidó en un pts en el pts de

y este comienzo de la andadura normativa sentó las bases y fue el inicio de un largo camino administrativo estudios informativos que ha mencionado el señor betoño

permisos sectoriales tramitaciones ambientales correspondientes en cada momento proyectos constructivos y la gestión de suelos expropiaciones y negociaciones

ha permitido la coordinación de esta infraestructura con los municipios acompasando los crecimientos urbanos

ferroviario suponía y cómo no ha permitido que otras políticas sectoriales observen cuáles serán sus nichos de oportunidad

egin du alderdi jeltzaleak madrilen definió el pts la cuestión territorial

para un desarrollo futuro algunos aspectos referentes a las entradas a las ciudades a las capitales y a la conexión con iparralde como recientemente y frecuentemente hemos oído

cuestiones se han alargado en el tiempo y todavía hoy son temas que requerirán de nuevos esfuerzos

hoy diciembre de dos mil veintiuno cuando ya han pasado veinte años desde ese inicio normativo por todo ello solo corroborar que la intención de euzko abertzaleak de seguir apostando por el proyecto

estos objetivos se han consolidado con el tiempo y han tomado una nueva actualidad y virtualidad el proyecto europeo no solo económico sino el objetivo

y los nuevos retos al combate de los efectos de la crisis climática precisan de nuevos modos de transporte de viajeros y cómo no de

en la necesidad de impulsar la ejecución del tren de alta velocidad y procurar la finalización de la obra y las superinfraestructuras y cómo no insistir

es inaudito que una infraestructura estratégica como es esta no sea objetivo

en avanzar en su construcción siempre ajustándose al marco competencial que nos acota y que implica que la financiación

pero buscando fórmulas que permitan avanzar fórmulas innovadoras propositivas y colaborativas con un único interés que es el interés general de la ciudadanía vasca

colaboración persigue un beneficio para euskadi siempre se ve impulsada por el convencimiento de que el tren tendrá un carácter tractor y reportará numerosos beneficios en términos de competitividad económica conectividad con europa el gran aporte que el transporte ferroviario supondrá hacia el objeto de descarbonización del transporte eta salatzen behin eta berriro abiadura handiko trenak

avance la encomienda de gestión de los tramos de entrada a las capitales

es un logro que permitirá dar estabilidad al proyecto y con ello pueda atender más rápidamente a las necesidades inversoras que este proyecto precise

esta infraestructura fue calificada como estratégica por europa hace casi treinta años y hoy sigue pendiente pero con menos incertidumbres con más certidumbres hay que coger la velocidad de crucero y hay que coger ya por fin

gracias señora presidenta buenas tardes señorías señores del partido popular una vez más sus propuestas llegan tarde y llegan tarde porque mientras ustedes proponían

así el viernes pasado se hizo público el acuerdo alcanzado entre el pnv y el gobierno de la nación para acelerar y materializar la llegada del tav a la comunidad autónoma vasca con este acuerdo el gobierno vasco asumirá en principio la gestión de la obra civil de esta infraestructura a través de una encomienda de la gestión algo que ansiaba desde el principio y que por fin han conseguido demostrando de cara a la galería su poder en las negociaciones con madrid pese a que aún habrá que esperar a ver cómo se articula esa encomienda cómo se pagará el tav y para cuándo está previsto que se inaugure dicha ruta

suponemos que el gobierno vasco ya habrá informado a empresas afines al pnv para ir preparando los condicionamientos

llevamos más de quince años de obras e inversiones económicas y la mejor de las hipótesis apunta a dos mil veintisiete como nos indicó el consejero arriola fecha que se prevé como la inauguración de la alta velocidad en el país vasco

muchas de las infraestructuras construidas han quedado obsoletas como por ejemplo los más de once túneles que se edificaron y en los que hay que cambiar las galerías de evacuación porque no cumplen la normativa de dos mil quince cuánto dinero de los vascos se ha tirado a la basura mientras se pelean por el tav millones de euros por otro lado tenemos a los señores de bildu que hoy nos presentan una enmienda que nada tiene que ver con lo propuesto por el pp en su moción

sepan ustedes que la riqueza de la tierra vasca pasa por estar interconectada con el resto del mundo no hiperconectada entre nosotras pero aislada del mundo que además evoluciona deprisa

eta en diciembre del dos mil ocho mataba a tiros al empresario ignacio uria por el único delito de ser consejero de una de las constructoras de la y vasca

habían irrumpido tres encapuchados en la empresa que gestiona el tav en gipuzkoa amedrentando y amenazando al personal que trabaja en la construcción del tav parece ser que son contrarios al desarrollo y progreso de la sociedad vasca la enmienda presentada por pnv y psoe es llamativa

pero no nos engañan sabemos que su interés era tener la encomienda de la gestión del tav y hasta que no lo han conseguido no han puesto más que trabas para su llegada a nuestra comunidad

finalizando en vox creemos que la llegada del tav es una excelente noticia para nuestro pueblo una tecnología que permitirá estar más cerca del conjunto de españa y que solo traerá prosperidad para nuestra tierra al facilitar las comunicaciones y la rapidez de las mismas pero tenemos clara una cosa

sí gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas efectivamente ser el

no permite poder añadir muchos más argumentos o por lo menos no nuevos pero en cualquier caso por empezar por el proponente

decirle que efectivamente en el primer punto de su iniciativa original se habla de la necesidad de plazos y ya es muy manido y se ha repetido que íbamos

décadas pero cuando se habla de cronograma entiendo por su intervención que a lo que se refiere es a un real real porque como bien se ha dicho ya por parte del portavoz de eh bildu

que se han puesto encima de la mesa pero también estos los ha ofrecido el partido popular

cuando ha ostentado el gobierno en el estado plazos compromisos de financiación y estos no se han cumplido en buena medida

culpar o echar culpas o asumir o no asumir mejor dicho las responsabilidades también propias en este caso creo que es bastante tramposo y cínico

iniciativa no la iban a plantear a la vista del anuncio por parte

de la semana pasada en relación con el compromiso alcanzado con el gobierno de españa bien es cierto que se ha incidido mucho en la cuestión de la encomienda de gestión

lo que da a entender es que los propósitos del pnv en relación con esta cuestión es básicamente lo que ya se ha puesto encima de la mesa y se ha planteado

que es seguir manteniendo la lógica de satisfacer a constructoras del país en lo que es la ejecución y el proyecto del tren de alta velocidad

planteada por eh bildu que sí creemos que tiene que ver con la cuestión y básicamente porque habla del modelo que es una cuestión también de fondo en relación con el tren de alta velocidad y cómo pensamos cada uno de nosotros y nosotras cuál debe ser el modelo de interconexión en este caso

y por nuestra parte sí consideramos que

una red de cercanías y no tanto tren de alta velocidad y en su caso que el tren de alta velocidad incorpore también lo que tiene que ver con las mercancías en buena medida

mejor dicho en mayor medida y esto en principio no es así lo que creemos que hubiese haberse

de cercanías o en su caso la ampliación de determinadas líneas de servicio de tren en nuestro

por tanto sí creemos que es oportuno hablar del modelo cuando se habla de esta cuestión como probablemente se nos eche en cara por parte del grupo proponente que nosotros también formamos parte del gobierno

pero desde luego en términos de capacidad de decisión aritméticamente no somos

de nosotros respecto a la cuestión de la sostenibilidad creemos además que un modelo en el que las líneas de cercanías y la intermovilidad en este sentido de intermodalidad en este sentido creemos que garantizan

la mayor fuente de contaminación es la movilidad y que efectivamente como se ha dicho en el proyecto de descarbonización y

efectivamente respecto a la movilidad hace falta hacer una gran reflexión y en este sentido desde luego el tren de alta velocidad no nos va

evitar a día de hoy el grado de contaminación que produce la movilidad en nuestro país sí desde luego el transporte colectivo en este caso otras modalidades

el tren de cercanías y respecto a las líneas de hendaya y de burgos sí que en este caso

hablado apenas creemos que hasta que esto no quede definido el proyecto del tren de alta velocidad en estos momentos parte cojo y creemos que tiene que quedar claro cuanto antes cuál es el papel que se va a jugar en la conexión con el estado francés porque si no es así

que se decía que la unión europea concedía a esta línea de alta velocidad por terminar y por motivar básicamente la posición de nuestro grupo en relación con las diferentes propuestas en relación con la original desde luego votaremos en contra porque consideramos que

cuando estos ya están puestos encima de la mesa lo que hace falta es en su caso cumplirlos

cuáles son los métodos para acelerar ya se le ha dicho si el método es no soterrar o en su defecto algún otro cambio estructural del proyecto que nos gustaría que definiese en su caso respecto a la iniciativa de bildu votaremos

habla de un modelo que compartimos y además porque las líneas concretas que figuran en la enmienda respecto a determinados proyectos también los hemos suscrito en el pasado y respecto a la iniciativa del pnv y el partido socialista no apoyaremos la iniciativa porque básicamente plantea como estratégico este proyecto y nosotros creemos que estratégicos son otros de cara a la descarbonización y también para ofrecer una movilidad

de otro calado en nuestro país y no desde luego en estos términos eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzunen txandara pasatuz

yo creo que el portavoz de los otros grupos que más me ha convencido o

el retraso de esta obra es lamentable lamentable y mire coincido con lo que ha dicho la señora lete es que es lamentable vamos a ver

había un compromiso había unas disposiciones presupuestarias y sobre todo hay una fecha y por qué es importante la fecha

para poder precisamente controlar al gobierno y la excusa del señor soto

pero somos la parte minoritaria o sea que en el consejo de ministros se votan las decisiones cómo va esto una cosa un poco extraña no pero en fin oiga pues yo no lo sé no entiendo mucho no me voy a meter ahí yo no diré usted me ha llamado tramposo y cínico hombre yo en su caso diré que usted es

porque ha visto lo que ninguno hemos sido capaces de ver en la propuesta de bildu que es lógica congruencia con lo que se está debatiendo aquí hoy porque se habla de una cosa totalmente distinta pero bueno oiga la generosidad de la mesa admitiendo este tipo de enmiendas a la totalidad oye pues es utilizada en muchos debates y sanseacabó pero bueno yo fíjese que no le imaginaba a usted señor soto como alguien que rechaza un buen debate pero bueno en fin

yo sí creo que hay un acuerdo sustancial en que los retrasos que está habiendo pues

a quien hay que achacárselos es al gobierno de turno que es incapaz de liderar un proyecto

pues claro que es un proyecto complicado pero tiene que haber un liderazgo y nosotros aquí proponíamos además que fuese un liderazgo por parte del propio gobierno vasco que junto con el gobierno de españa y el resto de administraciones pues llegue a unos acuerdos llegue a un acuerdo de verdad y que un acuerdo que sea de verdad

y claro que con unas fechas es que si no hay fechas no se puede controlar al gobierno es que si no es lo de siempre es ya iremos viendo oye vamos avanzando y haremos lo posible oiga

o como dice la señora san josé lo antes posible pues hombre sí claro claro oiga ojalá que mañana y mire que el señor sánchez no es santo de mi devoción ojalá mañana

fenomenal oiga fenomenal estoy hasta aplaudiéndole yo ahí en la entrada

pero oiga es que yo creo que lo que no entiendo es esto de la negativa a presentar o a establecer una fecha con un programa razonable yo no sé si es que pretenden que sea una sorpresa

que esto va a ser una cosa que es imposible o que de cumplir sobre todo porque entiendo que es que lo que desgraciadamente aquí se está viendo es que parece que la llegada del ave está dependiendo de unos equilibrios políticos a la hora de aprobar presupuestos en madrid

no hay que olvidar señorías que lo importante es insisto otra vez la conexión con burgos esos noventa cien kilómetros más o menos que oiga eso también cuesta un dinero

pues calculo que andará por esa cantidad aproximadamente y eso es lo que hace falta presupuestar a eso es a lo que hace falta comprometerse la propia señora san josé lo ha dicho

esperemos que se firme cuanto antes en el caso de bizkaia de bilbao o sea que me da la razón claro es que

lo que es objetivo pues es difícil discutirlo no la señora san josé hablaba de decisión voluntad política parafraseando al señor arriola que por cierto

que el propio nombre del proyecto pero bueno decisión voluntad política esfuerzo inversor que sí todo eso está bien pero hay que hacer una cosa muy importante que es hacer los deberes hacer los deberes y para hacer bien los deberes hace falta una planificación

unas partidas presupuestarias y hace falta un compromiso interinstitucional y no estar aquí todo el día con que si no

es que así no hay manera de avanzar sencillamente y sinceramente con esto

señora san josé si nos quiere convencer de que el gobierno lo está haciendo fenomenal con esto pues no es que yo creo que no ha convencido ni a su socio porque ya le ha dicho que es que es lamentable así que hombre

tengo ya curiosidad por ver qué nos plantea la segunda parte de su intervención porque usted siempre reserva la segunda parte para dar un poco la parte interesante a ver lo que nos cuenta en esta segunda parte porque desde luego la primera no nos ha dicho nada más de que ya iremos viendo que ya iremos haciendo que el gobierno está haciendo mucho y ya le digo es que yo creo que no ha convencido

ni a su socio de gobierno y señora martínez que el pnv se va a llevar la medalla

qué pasará con esto gracias señorías eskerrik asko gordillo jauna

horra bere aipua cuándo vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y tanto dinero

poco menos que un bidegorri un bidegorri para que me entiendan los oyentes es una ruta de bicicletas una carretera de bicicletas porque las vías no están puestas

no tenemos unión con la meseta bien hecha con burgos esto es un auténtico desastre

y tiempo y este es un proyecto que se está ejecutando en sus distintos tramos muchos de ellas finalizadas otros bastante avanzados y otros ciertamente con más demora

de la que a todos nos gustaría y aquí debemos hablar

entre otras ha tenido el ataque de la banda terrorista eta y esto no es más que un hecho

y que no se puede restar gravedad a lo que pasó durante años los terroristas amenazaron extorsionaron a las personas y empresas relacionadas con el tren de alta velocidad

como también lo es que a pesar de las amenazas y de que todo el gobierno

fue amenazado por eta fuimos capaces con el consejero arriola a la cabeza por eso

de poner en marcha la primera encomienda de gestión del ramal guipuzcoano en su conjunto licitando y adjudicando todos sus tramos

los retrasos atribuidos a actos de sabotaje y de hostigamiento

con las obras del tav las empresas constructoras y o sus trabajadores hablaba el señor fernandez de betoño de la gestión del tramo guipuzcoano de la

a treinta de septiembre de este año pues usted en esos doscientos y pico millónes

reajustes impositivos de iva que bueno que ese es un tema contable que no tiene que incluirlos y también la figura

ni tampoco las revisiones de precios porque esa es una figura

yo creo que si hablamos de unas desviaciones de un seis por ciento estamos hablando de una buena gestión teniendo en cuenta la envergadura y complejidad de las obras y que

estamos hablando de un total de treinta y cuatro túneles y treinta y dos viaductos está claro que este es un proyecto que nunca le ha gustado a eh bildu ya lo sabemos todos

todos los elementos e infraestructuras en euskadi que tienen o que caminan hacia la modernidad en fin ya sabemos que a pesar de que es contrario a estas infraestructuras luego

las utilizan y a mí me gustaría que los que se colocan detrás

en hacer realidad este proyecto porque ambos los que lo discuten han dado un paso importante apoyando los presupuestos generales del gobierno de españa que financia la y vasca lo cual

señor soto muy a su pesar

del gobierno de españa y durante esta legislatura pues es intención del señor arriola dar un impulso sobre todo a la solución de los accesos e integraciones

de vitoria gasteiz y bilbao y cuyos estudios informativos se encuentran en fase de tramitación ambiental repito y sí que hay liderazgo señor gordillo aquí sí que hay liderazgo porque es incontestable el compromiso del gobierno de españa y el gobierno vasco para la llegada del tren de alta velocidad de forma soterrada a las ciudades de vitoria y bilbao y su afán por

cuanto antes de la nueva infraestructura ferroviaria va a ser una realidad la llegada del tav así lo dijo la ministra de transportes y es una realidad incontestable el liderazgo socialista en este proyecto

del gobierno de españa del partido socialista de euskadi y del gobierno vasco para que de alta velocidad sea una realidad estamos aquí para acercar posturas pero ha sido imposible

votaremos la enmienda a la totalidad que hemos presentado junto con nacionalistas vascos muchas gracias eskerrik asko san josé andrea euzko abertzaleak

yo creo que sobre ese prisma hay que analizar esta infraestructura sobre el prisma del ámbito europeo la cohesión interna está analizada en otros aspectos

haya defendido en madrid de un modo constante e incansable la ejecución de la infraestructura constante e incansable ante gobiernos centrales que han hecho una apuesta templada templada con respecto al tren de velocidad alta

articulación del corredor atlántico europeo creo que en este momento estamos en un punto de inflexión en la materialización de la infraestructura gracias a los acuerdos adoptados en lo que a las propuestas que han hecho el resto de los grupos

lot ley de ordenación del territorio arabera garatu dira horren arabera

benetan ez dut ulertzen korapilo hau ez dut ulertzen apuntan a que las inversiones hay que reforzarlas en la cohesión territorial interna en eso también el pts aporta y también se ejercen

son infraestructuras que se siguen utilizando y se siguen invirtiendo sobre ellas la infraestructura del tav es complicada es complicada es innegable gipuzkoa es muy complicada zuk betoño jauna badakizu

conocéis lo padecieron en deskarga padecieron su grupo y

ejecutar algo en gipuzkoa no fue capaz ni la ordenación territorial ni el urbanismo ni la participación ciudadana y por supuesto tampoco la gestión de solucionar el problema o sea que doce años

todos los tramos en los que sí se ha ejecutado en plazo mucho más razonable en cuanto a la propuesta que nos hacía el pp

y acelere el proceso para la realización de los proyectos del soterramiento realmente señor gordillo resulta una obviedad una redundancia no parece necesario instar al gobierno a hacer algo que ya hace que ya hace el gobierno y los partidos que lo sustentan

no sé muy bien cuál era el objetivo de la moción probablemente bueno podríamos estar de acuerdo en muchísimos puntos pero no creo que en nuestro hacer parlamentario esto aporte nada añadido a lo que el gobierno ya hace en este momento no hay una propuesta que explote

nuevos nichos de trabajo evidentemente le invito a que hagan esa propuesta y la analizaremos conjuntamente quizás haya priorizado y de esto

que no tenían el valor estratégico que tiene la pieza de la y vasca en el resultado final del corredor atlántico

pero probablemente en este apartado usted y su partido sepan mucho más que nosotros que yo

y el gobierno que está gestionando en este momento en materia ferroviaria